el museo guggenheim bilbao es un museo particular que aúna

con una capacidad reconocida indiscutible para generar economía en el entorno en hostelería

una generación de producto intangible importante y el museo constituye un elemento importante en la recuperación de bilbao deprimida en los años mil novecientos ochenta por una profunda reconversión de su industria

en bilbao no puede ser sino extraordinariamente positiva a niveles diferentes económicos urbanísticos

de la ciudad y del país y también culturales guggenheim bilbao es sobre todo coherente en sus resultados con la razón y sentido que lo inspiraron el estudio de viabilidad que hizo la firma peat marwick señalaba en su introducción como razón fundamental

para la creación del museo los intereses y recursos de cada una de las partes bilbao tenía el deseo y la necesidad hay que decirlo de un estímulo cultural para la economía local y regional así como los recursos para financiar la operación la solomon guggenheim tenía abundancia de fondos artísticos experiencia en programación y necesidad de ampliar su mercado de ventas las necesidades y recursos de las dos

la cultura era el producto pero la economía era el objeto al cabo de los años la economía ha quedado más que satisfecha y nadie podrá dudar de que el producto

digo esto porque me parece importante valorar el proceso de gestación de aquel acuerdo entre las instituciones vascas y la fundación guggenheim

están contenidos en ese acuerdo inicial por primera vez en la historia

una sucursal y cobrar una cantidad por ello en concreto fueron veinte millónes de dólares los que pagaron las instituciones vascas en dos plazos entre mil novecientos noventa y dos

las condiciones del acuerdo entre las partes que determinan la relación de los socios hasta hoy y el funcionamiento del museo fueron establecidas unilateralmente por krens

sin que las pocas demandas de modificación expresadas desde la parte vasca tuvieran éxito alguno por su parte las instituciones vascas gobierno vasco y diputación foral de bizkaia formularon el posible acuerdo desde una dimensión

económica al punto de que fueron los responsables y técnicos de los departamentos de hacienda los que condujeron este los de cultura se incorporaron más tarde y muestra de esto es el hecho de que el guggenheim bilbao solo ha tenido un director de su creación

master en gestión y negocios pero en absoluto experto en temas de cultura al menos en origen

sobre todo si tiene en cuenta el desequilibrio manifiesto de la negociación de la relación y del acuerdo entre las dos partes pero aunque

vamos a ver cuál es la situación ahora que toca renovar el acuerdo el acuerdo se sustenta en el procedimiento de gestión del museo hasta hoy

la función de dirigir el museo en su conjunto de hecho

que la fundación solomon administrará y dirigirá el museo

así dirigió el conjunto de las obras de construcción del edificio ha dirigido y dirige la gestión de las colecciones y de la programación artística

las administraciones vascas pagaron hasta la apertura del museo cuatro coma seis millónes de dólares a la fundación

desarrollo y construcción en cuanto a la colección propia del museo la tenedora formada por las dos instituciones vascas soporta económicamente las adquisiciones que se hacen a propuesta de la guggenheim de nueva york desde los inicios se viene aportando anualmente

las administraciones vascas no se reservaron más protagonismo que el de pagar la factura por eso se constituyó una ponencia la pasada legislatura

guggenheim con vistas a la renovación en dos mil catorce del acuerdo porque después de los años igual se puede aspirar a algo más como decía el señor barrio también por ejemplo según lo apuntado

en el conjunto que si bien suponen un espaldarazo para la economía del museo

nos hace pensar que para la ciudadanía que vive con el guggenheim bilbaíno este es poco más que un objeto eso sí

aunque no lo visiten nunca es discutible que la potente red internacional guggenheim haya servido de manera suficiente para la proyección del mundo artístico y creativo vasco

o de consagrados como cristina iglesias y poco más hay que dotarse creo que conviene dotarse de expertos de contraste por ejemplo en la política de adquisiciones distintos de los de la fundación de nueva york en resumen

tomar el mando del museo bilbaíno en la parte que legítimamente corresponde incluso más habría que ver cómo implicar más al guggenheim bilbao

y habría que borrar esa impresión de que este como se ha dicho otras veces es un enorme árbol debajo del cual crece poca hierba

lo recogen las recomendaciones de la ponencia por eso

que el objetivo de la negociación con la fundación solomon es fortalecer los intereses de euskadi y abandonar el carácter de franquicia que de hecho tiene actualmente

para este museo y para la política cultural vasca que la renovación de los acuerdos con la fundación solomon reequilibre las capacidades de actuación de cada parte así que por eso

para la transacción que hemos alcanzado el grupo populares vascos y el grupo socialistas vascos porque creo que es

las conclusiones de una ponencia que ha trabajado intensamente durante año y medio aproximadamente en la que han aportado sus opiniones y valoraciones

directores de museos exconsejeros artistas una pléyade de personas con un

el listado lo veríamos en el ámbito si de ese conjunto de reflexiones votada favorablemente en este parlamento prudentes y que miran al futuro al desarrollo como decía

en su entronque en euskadi y en su auténtica proyección internacional desde euskadi si miramos eso creo que lo que dice

las recomendaciones de ese informe para llevarlas así a la negociación con la fundación solomon es vital para la cultura

moción que hoy nos trae aquí he comprobado que en la anterior legislatura una constante amenaza para el museo guggenheim bilbao sobre todo por parte del gobierno vasco como del contenido del documento de la ponencia ya se ha hablado

al motivo por lo que nos ha traído aquí esta moción voy a hacer un relato que va a ser breve cuando el señor viceconsejero de cultura se da cuenta que debido a la estructura organizativa del guggenheim no iba a poder imponer a su antojo en la actuación del museo buscó un modo de modificar dicha estructura

una ponencia en este parlamento de forma que pudiera tener una coartada por un apoyo parlamentario que entonces era claramente mayoritario y además hacer desfilar por aquí

con el impacto mediático que eso le daba claro esta ponencia ya tenía el texto básico el texto fundamental escrito de antemano antes de iniciarse

el señor viceconsejero no dejó de ir lanzando los mensajes que luego tenía que recoger esa ponencia pero a pesar de todo como el tiempo iba corriendo su frustración era tal que no se pudo aguantar y en lanzó una serie de ataques al propio museo guggenheim por el que fue censurado por todos los elementos de la cultura del país incluso

del propio partido socialista claro aunque el interés del señor viceconsejero no era otra cosa que el control del museo guggenheim mientras tanto sucedió que se planteó hacer otro guggenheim en helsinki

el museo de bilbao el guggenheim bilbao se tenía que posicionar porque tenía derecho de veto como hay informes en ese sentido y posicionamientos claros por parte del gobierno había pocos porque su dedicación era para otra cosa

informes a un experto para poder posicionarse tengo que apuntar que

se pusieron de acuerdo para posicionarse de cara al tema del museo

yo creo que suficientemente clara y potente quiero destacar algunas cosas del informa del experto en dicho informe se dice que el museo guggenheim bilbao es un proyecto de éxito y que quizás cabe añadir

y a priori se identifican tres líneas de trabajo importantes que es realizar propuestas más arriesgadas en la represión y difusión de las artes visuales adoptar un papel más

sus programas para mejorar su impacto en el ámbito de proximidad dice también

con experiencia demostrada en la gestión de grandes proyectos

rol más proactivo en el conjunto de la red y que se reivindique como modelo de gestión de éxito

en este punto tengo que recordar que el acuerdo que se renovará en dos mil catorce que se supone que es el motivo por el que se trae aquí esta moción

es el de gestión de mil novecientos noventa y cuatro y no otro ante un informe tan demoledor respecto a la actual gestión lo coherente hubiera sido que el documento a la ponencia hubiera recogido las aportaciones de los comparecientes

el documento de posicionamiento ante el museo de helsinki

y el gobierno vasco y aportar un documento de consenso sin embargo presentaron un documento que introduciendo casi con calzador algunas propuestas de mejora realizadas tanto el citado especialista como de los ponentes para darle una cierta coherencia formal

como por la actitud sincera creo de upyd y aralar ante la ponencia el

antes de iniciarse la ponencia para ser instrumentalizado por el departamento de cultura es un documento lleno de inexactitudes

como al propio museo y a sus patronos yo creo que han perdido o perdieron la oportunidad de hacer un documento que recogiese realmente las aportaciones de los comparecientes y se hizo

hoy nos piden que avalemos este documento que lejos de generar acuerdo genera división y que en absoluto nada de cara a la negociación para el acuerdo de gestión deberá firmarse el dos mil catorce porque no es precisamente el grueso de la ponencia que ya estaba firmada lo que aporta sino las últimas cositas que se introdujeron algunas de la cuales y que ya están recogidas

en el documento que comentaba nosotros lo que décimos es que hay que atender la propuesta de mejora realizada realmente por los ponentes y por eso hacemos la enmienda en la que décimos que el parlamento vasco considera de gran valor las aportaciones realizadas por los comparecientes en la ponencia

e insta al gobierno vasco a que concreta las consideraciones y recomendaciones realizadas

interpretándolas e integrándolas en una propuesta de negociación que se refiera a lo que se va a negociar y no meter otros elementos de interés

sí gracias presidenta nosotros obviamente votaremos a favor de la transaccional

como no podía ser de otra manera puesto que nosotros votamos a favor de ese dictamen votaremos también a favor de esta transaccional firmada entre el grupo popular y el grupo

de esa ponencia durante la pasada legislatura y lo cierto es que podemos decir con

que todos los que participamos en ella realizamos un gran trabajo realizamos todos nosotros un trabajo interesante tanto los representantes de los grupos parlamentarios como cada uno de los comparecientes cada uno de los cuales realizó libremente sus aportaciones una ponencia que tenía como objetivo analizar y evaluar la trayectoria del museo guggenheim bilbao un trabajo que queríamos que sirviera para el mejor abordaje posible de la renovación del acuerdo firmado entre el gobierno vasco y la diputación foral de bizkaia

nos plantea que este parlamento renovado asuma las consideraciones de aquel dictamen

nosotros ya digo que obviamente estamos de acuerdo con este planteamiento

básicamente de acuerdo con el borrador del informe inicialmente planteado por la ponencia sin embargo vimos que había margen para que pudiera mejorarse y efectivamente de buena fe nosotros realizamos nuestras aportaciones a través de cincuenta enmiendas parciales no hubo ningún grupo que realizara tantas enmiendas incluso hubo algún grupo que prácticamente no

con el objetivo de tratar de mejorar ese borrador porque según nuestra opinión

tenían esas cincuenta enmiendas planteadas por upyd un triple objetivo

hacerlo más entendible corregir determinadas expresiones e incluso en algún caso corregirlo ortográficamente por otro lado suprimir determinadas referencias al grupo parlamentario nacionalistas vascos e incluso determinada referencias a la diputación foral de bizkaia que inicialmente se realizaban en ese borrador

de lugar y no tenían sentido en el informe final que la ponencia

mejorar determinadas expresiones que en nuestra opinión eran excesivamente categóricas o tajantes visto lo que los diferentes

habían planteado y habían argumentado finalmente se nos aceptaron prácticamente todas las enmiendas parciales y las que no fueron aceptadas directamente se transaron con el grupo popular vasco y grupo socialista

problema finalmente se aprobó un dictamen muy interesante que recogía y recoge una serie de recomendaciones creo que no es cuestión de reabrir el debate ya se hizo ese debate al menos por nuestra parte no queremos reabrir el debate porque nosotros apoyamos aquel dictamen recomendaciones y se trata en nuestra opinión de observar ahora si este parlamento renovado las apoya o no nosotros lógicamente las apoyamos trabajamos en la ponencia hicimos nuestras enmiendas firmamos el dictamen lo votamos y se aprobó en la comisión

veremos ahora si efectivamente hay un parlamento renovado que vuelve a apoyar este dictamen pero no creo que sea el caso ahora de reabrir nuevamente

desde el reconocimiento expreso y claro de que el museo guggenheim constituye una realidad exitosa para euskadi

proyecto de mayor rendimiento en cuanto a inversión pública de los últimos veinte años con nuestras aportaciones y recomendaciones planteábamos posibles mejoras que garantizasen

en el futuro no podemos olvidar que las circunstancias han cambiado y han pasado casi veinte años desde el acuerdo del veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro y tampoco podemos olvidar que todo proyecto es mejorable y también este

este dictamen realiza una serie de recomendaciones que en nuestra opinión son muy interesantes

que esta ponencia tuviera el dictamen escrito de antemano como ha dicho el portavoz del grupo nacionalistas vascos nosotros no lo vemos así en absoluto creo que es una

no querría decir que es una falsedad pero nosotros no consideramos en absoluto

estuviera ya prescrito me parece que decir esto es despreciar el trabajo que desarrollamos en la ponencia hicimos un buen trabajo escuchamos a muchísimas personas

recoge los asuntos mayoritarios fue eso lo que básicamente se planteó y ahí está recogido en el dictamen y ya digo que hubo otras opiniones por supuesto que sí pero minoritarias en todo caso

estuviera escrito en absoluto fue producto de un buen trabajo desarrollado por todos los grupos y por los entendidos en la materia durante largos meses a partir de ahí surgen una serie de recomendaciones

y el museo guggenheim bilbao que el museo establezca alianzas con otras instituciones y mantenga una capacidad de interlocución propia en el escenario internacional

que la fundación se comprometa a cumplir con la disposición acordada de dotar al museo guggenheim de una colección de arte vasco y español contemporáneo adquirida con fondos

que la colección propia adquirida con fondos públicos tenga sentido y coherencia propia que dicha colección propia tenga una colección de arte vasco significativa

mediante su proyección exterior se planteó que había que estudiar la posible separación de la gestión del museo guggenheim de la dirección de estrategia global de la fundación se planteó la necesidad de crear una dirección artística y se planteó también

con las universidades vascas se planteó también que el patronato debería estar abierto a artistas críticos e investigadores expertos vascos y foráneos y lógicamente se señaló la importancia que tenía y que sigue teniendo que haya el mayor consenso posible

yo creo que estas recomendaciones son perfectamente razonables y que pueden tener el apoyo de este parlamento renovado desde luego lo tuvo ya en aquel momento aquello ya se debatió y se votó y fue este dictamen y estas recomendaciones lo que la comisión de cultura aprobó amplia mayoría en todo caso pensamos que la ponencia parlamentaria que tenía como objetivo analizar y evaluar la trayectoria del museo cumplió su labor y realizó un gran trabajo un trabajo que queremos sirva para el mejor abordaje posible de la renovación del acuerdo firmado entre el gobierno vasco la diputación foral de bizkaia y la fundación salomon

ahí está el dictamen vamos a ver señor portavoz del grupo nacionalistas vascos no creo que el dictamen sea una verdad absoluta y seguro que hay margen para la crítica o el disenso pero creo que en general recoge lo fundamental del asunto y el gobierno vasco debería tenerlo en cuenta creo que son todas propuestas perfectamente razonadas y razonables y creo que el grupo nacionalistas vascos también debería reconocer que puede asumir perfectamente

recomendaciones recomendaciones y dictamen elaborado a partir y después de haber escuchado a efectivamente decenas de artistas investigadores galeristas profesores directores de museos ex responsables institucionales

en fin este es el dictamen que se aprobó nosotros lo aprobamos hoy también pensamos que es buen momento para instar al gobierno vasco a que lo tenga en cuenta y a que lo asuma y veremos si en este parlamento renovado

o no que asume estos planteamientos nosotros en todo caso los asumimos sin ningún tipo de dudas son los nuestros son los que pudimos trabajar son nuestras aportaciones y

señora presidenta pues bien quiero agradecer al señor maneiro a la señora ubera

su disposición al acuerdo y a ver que estamos hablando de algo positivo desde luego también quiero hacer un recuerdo algunos de los parlamentarios que participamos en la ponencia estamos aquí pero otros no es decir que también hicieron un buen trabajo el señor atutxa que presidió la ponencia o la señora pérez fuentes o el señor basabe que aportó y tuvieron enmiendas y yo creo que fue un trabajo parlamentario bonito y además bueno para el país y yo creo que eso hay que reconocerlo

un trabajo interesante a pesar de esos recelos del pnv mire señor arieta ya no está el anterior viceconsejero

algunas de las afirmaciones que realizó en aquel momento también lo pusimos de manifiesto pero ni era parlamentario ni participó en los trabajos de la ponencia

la atención de lo relevante no desvíe la atención de lo relevante el dictamen por supuesto que no estaba hecho con esa afirmación usted está descalificando

la participación de quienes desde el punto de vista de expertos de directores de museo

de galeristas de artistas participaron en esa ponencia y sus palabras y sus reflexiones se materializaron en las conclusiones de esa ponencia yo creo que en ese sentido usted es injusto al decir que el dictamen estaba hecho no estaba hecho se trabajó duro

y además usted se va a dar cuenta usted se va a dar cuenta de que lo que se habló en esa ponencia son cosas que se van a tratar por la parte vasca

la señora consejera y su equipo van a tener con el diputado de cultura de la diputación

se van a tratar sí o sí todas esas cuestiones que hemos planteado así que yo creo que

descalificar ha tratado de buscar el tema del guggenheim helsinki que es un tema que fracasó

para este debate no pero este debate es completamente distinto estamos hablando del museo guggenheim bilbao

al informe de aquel experto que hizo un rol más proactivo en el museo guggenheim pues eso es lo que busca esta

del parlamento vasco eso es un rol más proactivo en la red guggenheim por parte del museo guggenheim bilbao eso es lo que buscamos precisamente y eso es en lo que queremos

usted ha dicho que el trabajo de la ponencia

para darle contenido político ideológico o por lo menos alguna tendencia o algún planteamiento alguna reflexión al gobierno vasco pero

si estuvieron aquí la ex diputada de cultura señora greaves

el ex diputado de cultura de la diputación señor uribe etxebarria no me diga usted que estábamos ninguneando

si sus principales actores durante estos últimos años en la fundación en el museo por parte de la parte vasca y por parte de esa parte de la parte vasca

de tratar de descalificar el trabajo sobre todo si es de descalificar hay que hilar fino y encontrar elementos importantes yo me quedo

de la consejera el pasado día para nosotros decía la creación de una ponencia en el seno del parlamento vasco con el fin de realizar un profundo análisis al objeto de alcanzar los mejores acuerdos de renovación posible para todas las partes y especialmente para la vida y bienestar de la ciudadanía demuestra

interpretándolas e integrándolas en una propuesta de acuerdo negociable para lo cual es necesario conocer

y con la que nosotros nos quedamos ese es el elemento fundamental reconocer el trabajo como lo hacía la señora consejera qué queremos y además por ejemplo sin ir más lejos el propio director el señor bidarte a preguntas periodísticas el acuerdo

el treinta de diciembre de dos mil catorce sobre qué base se deberá negociar

fue una decisión ambiciosa hace veinte años pero sigue estando vigente además lo que hoy es

con la fundación y lo que era el bilbao de hace veinte años no tiene nada que ver de todas esas cuestiones hemos estado hablando en la ponencia y

no es lo mismo y el contexto en el que se movió la negociación primera

pero queremos aportar desde el parlamento vasco tenemos derecho señor arieta qué mal llevan ustedes que nos preocupemos por el museo guggenheim bilbao

que el guggenheim bilbao es patrimonio del pnv y no el guggenheim bilbao es patrimonio de todos los vascos

bai presidente andrea yo no voy a repetir la

la comparto plenamente pero la comparto porque parlamentariamente es inadmisible que un representante de un grupo político

validez al trabajo de una ponencia realizada con seriedad durante año y medio por el conjunto de la cámara y aprobado en ella no criticando su contenido sino con una descalificación genérica e incluso irrespetuosa eso

parlamentaria que se critique como se quiera el contenido con el que

toda una ponencia que ha trabajado año y medio de la forma en que aquí

señor arieta araunabeña dice que el contenido no merece la pena el de las resoluciones de esta ponencia

le voy a preguntar si merece la pena entresacando algunas de las resoluciones el que se establezca una colaboración paritaria

la fundación solomon y el museo guggenheim bilbao si le parece una nadería una nimiedad que la

con la disposición acordada de dotar al guggenheim bilbao de una colección de arte vasco y español contemporáneo adquirida con fondos de la fundación solomon

del museo guggenheim bilbao de la dirección de estrategia global porque esta convergencia de funciones en la misma persona no sé si esto le molesta pero es un hecho

dice una resolución o que se pida mayor colaboración con las universidades vascas especialmente con la facultad de bellas artes de la universidad del país vasco

en el tejido cultural vasco y la investigación en el ámbito cultural o

solucionar antes las discrepancias internas para unificar criterios es necesario por tanto abrir un proceso de trabajo previo y sin urgencias mediáticas ni partidarias

responsables y que debe realizarse un profundo esfuerzo para otorgar en la negociación de dos mil catorce más fuerza y autonomía a la parte vasca como garantía para prolongar el éxito y consolidar su referencial internacional

pero una nadería no será despreciar lo que acabo de leer que es parte del contenido de la ponencia me parece

haya cada uno y solo quería decir que a veces se plantea en esta cámara por algunos grupos que no se vota una transacción con eh bildu

ya pero es que lo que se vota aquí es un impulso de actuación del gobierno es un mandato de actuación al gobierno es el gobierno quien va a aplicar lo que se aprueba aquí no es

no quiere votar las transacciones que firme bildu está en su derecho pero debe tener al menos política de defenderlo en esos términos por una cuestión ideológica pero no echar culpas de forma mezquina a los demás de que firmen transacciones por el bien de la ciudadanía
por mejorar el bienestar de los ciudadanos y por el progreso en euskadi gracias eskerrik asko

señor barrio si quiere llevarme la contraria utilice sus argumentos pero no ponga en mi boca cosas que yo no he dicho yo no he despreciado las aportaciones de los ponentes
y eso quedá clarísimo en la enmienda que hemos presentado está escrito por lo tanto diga usted lo que quiere porque la enmienda está escrito y la puede leer quien quiera

en segundo lugar cuando usted dice que habla de consenso de que la diputación foral de bizkaia que ha estado presente porque han podido comparecer

si ustedes se negaron a que la diputación foral de bizkaia que es otros socio igual que el gobierno vasco

se negaron a que presentase un informe si solo presentó informe el gobierno vasco el informe de partida y no pudo presentar en la diputación foral de bizkaia

qué es eso a parte señor barrio todos lo hemos escuchado cantidad de veces cuál es su opinión sobre la diputación foral de bizkaia y si alguien quiere saberla yo

a que mire todas sus intervenciones respecto al museo guggenheim por cierto también es interesante ver la posición que usted mantuvo sobre el museo

usted sí ha dicho lo que realmente piensa y es ese complejo que tiene cuando ha dicho siempre el pnv cree que esto es todo de ellos

todo lo demás no es más que pajita pajita para esconder al final lo que usted realmente piensa y lo que a usted le ha hecho actuar en este caso de correveidile del señor rivera ni más ni menos señor barrio

para decir usted que el viceconsejero no estaba no ha dicho no ha hecho pero si usted hoy mismo ha intentado meter de refilón

el señor rivera para atacar al guggenheim en brasil lo que pasa que los ha utilizado con otro sentido

usted señor reyes cuando ha estado hablando de los dineros que ha tenido que pagar etcétera bien luego que me hablen de consenso cuando se niegan a que la diputación foral de bizkaia

yo no pongo en ninguna duda el trabajo de la ponencia señor maneiro sino el documento de conclusiones y la dirección del mismo

mire usted mismo ha dicho que había un informe previo con el que estaba prácticamente de acuerdo

al pnv y a la diputación foral de bizkaia por lo tanto esto no lo he dicho yo esto lo ha dicho usted y por mucho que lo nieguen tanto el partido popular como el partido socialista nosotros señor maneiro si que planteamos enmiendas sesenta

cuarenta y ocho no fueron tenidas en cuenta en cuanto a lo de renegociar de tú a tú sí en cuanto a tener más peso desde bilbao sí

entonces este tipo de cuestiones hay que matizarlas pero esto es lo que está todo mezclado en el informe nosotros lo que no queremos es que se meta cizaña el problema no está en lo que dijeron los ponentes sino en el texto que

y yo le digo que poca base es la que se recoge sobre lo que dijeron los ponentes y mucho del informe previo que hizo el gobierno y que no solo ninguneaba al otro socio la diputación foral de bizkaia

y extrañamente además no se le pidió ningún otro informe a la diputación no hacía falta por lo visto nosotros como se ve en la enmienda insisto no ponemos en cuestión la aportación de los ponentes ni la buena fe

en la ponencia de hecho la señora ubera también ha planteado un poco por dónde van sus planteamientos ella considera de que así defiende mejor apoyando esta ponencia pues bueno

pero yo lo que estoy poniendo en tela de juicio es la actuación desde el primer momento de los señores del pp y de los señores del psoe

esta moción aquí una moción que insisto no aporta absolutamente nada

para lo que se va a negociar y hoy la moción se trae justificando en que en el dos mil catorce se va a negociar no se dice hay otras cosas que son aprovechables claro

las que también decía el experto y que no tengo ninguna duda que tanto el gobierno como la diputación
las apoyarán y las tendrán en cuenta lo que no es aceptable es lo otro muchas gracias eskerrik asko

maneiro jauna zurea da hitza gracias presidenta desde el escaño con su permiso para decirle al portavoz de

que yo lo que he dicho es que no había redactado nada de antemano yo digo que lo que hubo allí fue un borrador de dictamen elaborado entre todos los grupos al que

tuvimos la oportunidad de enmendar y nosotros realizamos nuestras propias enmiendas así como lo hicieron el resto de grupos y que el dictamen definitivo recoge expresamente recoge perfectamente lo fundamental de lo que los diferentes entendidos en la materia plantearon durante esto es lo que digo yo no había por lo tanto redactado nada de antemano había un borrador de dictamen elaborado entre todos los grupos que se podía enmendar se enmendó y se mejoró se mejoró sustancialmente y se aprobó definitivamente ese que nos parece perfectamente razonable y defendible y votable

señor portavoz señor arieta no sea se lo digo sinceramente no sea tan injusto con el trabajo realizado en esa ponencia no sea tan injusto

así mismo que posteriormente se supo que luis enrique hellín era en realidad

ex militante de fuerza nueva y jefe del grupo cuarenta y uno del batallón vasco español condenado a cuarenta y tres años de cárcel por el secuestro y asesinato

así como por un delito continuado de depósito de armas de guerra y tenencia de explosivos por seis delitos de falsificación de documentos de identidad y por un delito de uso público de nombre supuesto de la citada condena

durante los cuales protagonizó varios intentos de fuga y un quebrantamiento de condena aprovechando un permiso penitenciario en el que se fugó a paraguay donde realizó trabajos para los servicios de vigilancia

formando agentes de ese gobierno en técnicas de espionaje en febrero del dos mil trece se han hecho públicas las relaciones que bajo el nombre de luis enrique hellín moro ha mantenido con altas instancias policiales

de la guardia civil e impartiendo cursos de formación para diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del estado